señora presidenta señores y señoras parlamentarias arratsalde on muy buenas tardes

he leído atentamente el acuerdo que han firmado ustedes que hicieron firmar ustedes al partido socialista de euskadi para incorporar al gobierno que pretenden ahora formar también he escuchado atentamente su intervención de esta mañana me permitirá que le diga que la intervención

a la junta general de accionistas en cualquier caso yo quiero comenzar

por el pacto que han alcanzado pocas veces alguien obtuvo tanto

se dejan ustedes tres viceconsejerías que tienen escaso peso político y consiguen que su socio que es por cierto el mismo de los últimos cuatro años con el que comparten sillones en diputaciones y ayuntamientos acepte su pensamiento único nacionalista y acepte su lenguaje único nacionalista a lo largo de todo el texto y hasta consiguen que acepte y que rubrique

no solo eso sino que además consiguen que el partido socialista de euskadi renuncie a los postulados que con tanto ardor y con particular enojo por parte de los representantes del pnv había defendido la señora mendia durante la pasada campaña electoral

el conocimiento del euskera como requisito para el acceso a la administración vasca

el rechazo que comparten a que desde las instituciones del estado se pueda invocar el artículo ciento cuarenta y nueve

que lo que atribuye es la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales la igualdad

la igualdad pero así con todo es más añaden una cláusula que les permite a ustedes defender en cada momento lo que les parezca y pactarlo con quien les convenga eso sí y esto no queda tampoco lugar a dudas en el texto de lo que se va a

es del reconocimiento de euskadi como nación y del derecho a decidir del pueblo vasco siempre dentro de la ley como cuando el plan ibarretxe y se lo hacen firmar ustedes al partido socialista de euskadi que se podía no haber puesto nada haberlo pasado por alto pero no

de la debilidad del socio dice la señora mendia que se trata de un acuerdo transversal que no sé muy bien qué significa siendo el caso

y desequilibrado a favor de las tesis más reivindicativas del pnv y dice también que es histórico

qué quiere decir cómo será recordado en qué historia de incertidumbre y de división nos puede meter como no sea porque en efecto los postulados que incorpora son los postulados históricos del pnv en sus peores momentos de ruptura con españa

confieso que me siento mejor tratado a nosotros nos echaron de la mesa de este parlamento pero no nos hicieron firmar ningún papel nos echaron entre todos del gobierno de vitoria

hoy podemos mantener aquí nuestro discurso político en defensa de la constitución y en defensa del estatuto con más fuerza que nunca en defensa de la unidad de españa

de nuestros derechos históricos en defensa de la concordia de esta sociedad plural que formamos los vascos con españa y con europa pero ahora que han expulsado al pp de cualquier ámbito de decisión política del que han podido expulsarle

se sienten ustedes ya con las manos libres para que esta legislatura no se les vaya en blanco y puedan poner a rodar su nuevo estatus de la mano de la mayoría soberanista

este es el compromiso central de su gobierno y es también la principal amenaza que afronta la sociedad vasca la que más pone en cuestión la estabilidad política de la que depende el progreso social y económico de los vascos las apuestas señor urkullu se dividen entre quienes mantienen que no van a ustedes a hacer nada más que marear la perdiz en una ponencia que no conduce a sitio alguno como ocurrió la anterior legislatura y los que sostienen

y que habrá un nuevo intento una vía vasca hacia la autodeterminación

que como dicen ustedes que todo lo harán al amparo de la legislación vigente no hay tanto de qué preocuparse una desconexión legal pactada y por fases

consolidando a cada paso el máximo poder posible en las instituciones políticas sociales y económicas un proceso donde lo importante no es

un espacio propio y diferenciado donde no quede vestigio de españa

donde las instituciones del estado no puedan velar por el cumplimiento de las leyes ni por la vigencia de la constitución cuando colisione contra la voluntad

el pnv un proceso sujeto siempre a la máxima aspiración de su centenaria organización política hacerse con todo el poder

que vista la experiencia catalana andan ustedes con las barbas a remojo en un amago infinito acechando la ocasión en que por debilidad ajena

hacia la independencia de euskadi solo que hay materias señorías de las que no podemos disponer quienes integramos este parlamento ni quienes presiden nuestros gobiernos

el único actor con capacidad de decisión son los españoles en su conjunto

y les confirmo que de esa obligación constitucional mi fuerza política hace causa y se siente garantía y que nos sentimos garantía y hacemos causa

frecuencia porque nada nos es más importante a nosotros que cuidar de la convivencia entre todos y de evitar las fracturas ciudadanas se da la circunstancia que tampoco es nueva de que este acuerdo político en el que se sustenta la investidura contado con bildu y en concreto con el señor

que ha sido recibido en las sedes de ambos partidos durante el proceso negociador y cuya impronta es notoria también en el programa que ustedes nos ofrecen en el día de hoy no tanto porque le hayan dejado meter la pluma en el acuerdo sino por todo lo que han procurado agradarle

y así en el diagnóstico sobre los problemas de nuestra convivencia en el país vasco eluden cuidadosamente hacer figurar a eta como una organización terrorista

en la situación de sus presos que cumplen condena como consecuencia de su actividad criminal como mucho se habla de la violencia de eta

y vulneraciones de los derechos humanos se vacía de esta manera de significación política a las víctimas de eta porque las víctimas del terrorismo de eta adquieren su verdadero significado no por el sufrimiento que han padecido que es terrible sin duda

sino por el objetivo político que perseguía eta cuando atentaba contra su vida

y ese objetivo era conseguir la independencia de euskal herria para imponer un proyecto de corte totalitario eso es lo que ha pasado en el país vasco y lo que hace diferente nuestra experiencia eso y que existe todavía una fuerza política con representación importante en euskadi

sino que busca contextualizarla para procurar la legitimación y que es la misma expresión política

y política al terrorismo yo reconozco que ustedes aspiran a que eta se disuelva

yo sé que ustedes están comprometidos con los derechos humanos y son activos defensores de los mismos pero no conviene olvidar que si eta no mata ya

de los terroristas sino porque fue derrotada por el estado de derecho por la movilización social por un acuerdo político que fue extraordinariamente eficaz por la labor de jueces ertzainas

guardias civiles y tantos servidores públicos y por la cooperación internacional y en efecto ha sido derrotada no era invencible y no puede pretender

o negociado ni mantener a sus presos sujetos a su disciplina

de colaboración con la justicia de reconocimiento del daño causado y de reinserción los vascos no le debemos nada a eta

o de una desviación interesada de responsabilidades se llegue a pensar que se quiere como pedía aitor esteban hace pocos días en el congreso durante la sesión de investidura ponerle un puente de plata a eta para que se disuelva siguen quedando rescoldos de odio en euskadi

una subcultura de intolerancia impermeable a las normas básicas de la convivencia democrática aflora a veces como hemos visto en hernani o en alsasua y debemos hacerle frente con determinación para que nuestros hijos

tanto todos así que señorías

un acuerdo político entre el pnv y el partido socialista de euskadi en el que bildu ha actuado como observador no es de extrañar ya venimos observando que en los gobiernos que comparten pnv y pse cuando suman la mayoría

el pnv y cuando no como es el caso de álava pues hace lo que dice bildu que es el que da la mayoría para aprobar las normas y los presupuestos yo quiero pensar

que mi confianza mengua según releo el acuerdo que han suscrito a estas alturas de mi intervención ya supongo que usted intuye que no me gusta

votaríamos en contra si estuviera permitido en el reglamento reconocemos su derecho a formar gobierno y reconocemos la legitimidad que le han proporcionado las urnas

y aun así le seguiremos ofreciendo voluntad de diálogo pero de un diálogo para la estabilidad política

que nace no solo de los acuerdos que serán obligados ante la mayoría insuficiente que representa su coalición de gobierno sino también tiene que nacer de la moderación y de la búsqueda de la centralidad

en la acción de gobierno de la estabilidad política se deriva la estabilidad económica y social algo imprescindible para una sociedad como la vasca que aspira a crecer activar toda su potencia para ser un territorio atractivo para vivir para invertir y para ofrecer a todos oportunidades

es el centro el espacio que buscamos para poder encontrarnos la moderación el territorio del respeto y la transacción

pero queremos también y echamos en falta en el acuerdo que han presentado un poquito más de ambición en la apuesta del gobierno porque en el apartado soberanista la ambición

pero en lo demás hemos encontrado poca cosa nueva mucha autocomplacencia una sucesión de planes sin concretar y muchos deberes pendientes y promesas incumplidas

diecinueve proyectos de ley lo cual quiere decir que viene otro nuevo periodo de sequía legislativa diecinueve proyectos para cuatro años de los que presenta siete se corresponde con proyectos que ya se tenían que haberse tramitado en la legislatura anterior

y en fin supongo que los demás son la novedad legislativa que traen y que presentan esta mañana en la cámara olvidan también otros compromisos que llevan largo tiempo pendientes como es

pongamos entonces que lo demás es novedad pero le voy a dar un dato para que tengan ustedes una referencia en galicia en el mismo tiempo de la legislatura pasada que coincidió en las mismas fechas se aprobaron cincuenta y cinco leyes le voy a dar una cita que seguramente le inquietará

y dice así el cómputo del número de leyes aprobado cada año es un índice habitual para valorar la gestión gubernamental de modo que cuando no se presentan proyectos de ley o su contenido carece de relevancia política o social se concluye que el gobierno no cumple con su misión

que el gobierno no cumple con su misión muy fuerte intente usted esta legislatura no tener que darse aludido por esta cita pero no solamente es en las leyes las inversiones que comprometen hace tiempo que debían estar hechas de lo mucho que han sido

en alguna ocasión tiene más de diez años las promesas concretas que ustedes fijan en su tiempo igual cosa pasa

y poca novedad mucha literatura pero poca concreción yo creo que se tienen ustedes que aplicar algo más

y le aseguro y se lo digo con sinceridad que si van ustedes en serio en lo que se refiere al bienestar de los vascos nosotros estaremos dispuestos a arrimar el hombro

el pacto que nos han traído hoy aquí el problema de euskadi no está en la estructura política del estado ni se va a resolver por desbaratar el sistema estatutario que es el área en el que más hincapié han mostrado en el documento que han suscrito

en que la población vasca es ahora la misma que había hace treinta y cinco años solo que más envejecida el problema de euskadi está en que la tasa de natalidad es un uno coma cinco punto inferior a la europea y la tasa de reposición es negativa

el problema de euskadi no está en el membrete con el que se notifica la pensión a sus perceptores

y las cotizaciones solo cubren el setenta y dos por ciento de las prestaciones

es del ochenta por ciento el problema de euskadi es que el déficit de las pensiones anuncia la dificultad para abordar el coste de los servicios sociales y la sanidad

de lo que se presupuestó ahora hace un año el problema de la sociedad vasca está en que las exportaciones han bajado un uno por ciento en lo que llevamos de año en un contexto de incremento nacional de la exportación en definitiva el problema que tiene euskadi está más de puertas adentro

y que por el contrario revela importantes lagunas de las que ustedes

a pesar de las oportunidades que brinda el régimen autonómico con más competencias de europa al contrario de lo que ustedes pretenden hacer creer el problema de euskadi no es su relación con españa el problema que hay que resolver en esta tierra es que como

usted mismo aplaudió cuando el exconsejero pedro luis uriarte presentó su informe el país vasco ha pasado de representar el siete coma cinco por ciento del pib español a representar tan solo

hasta ahora y todo eso no se resuelve echando la culpa a los demás especialmente cuando se vive del impulso que para la recuperación económica

y la política económica promovida por el gobierno de españa que han hecho que nuestro país sea hoy

sin duda es importante para los vascos que ese impulso se mantenga y conviene al interés de su gobierno señor urkullu contribuir a que eso sea así

la innovación y el desarrollo social en el conjunto de españa para ser un lugar atractivo para el talento

usted lo pedía que tiene que ser compartido y que necesita asentarse sobre una cultura de concertación que en nuestra tierra pasa por horas bajas por eso no vamos a escatimar el apoyo a cuantas medidas sean eficaces para hacer de euskadi un lugar más competitivo y más abierto pero tienen ustedes que cambiar recuperar de verdad la inversión productiva que abandonaron los últimos años

no a las jubilaciones del sector público nuestro proyecto quiere recuperar el protagonismo de la iniciativa de los ciudadanos para fomentar de forma decidida

necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos de vida hemos dejado atrás una legislatura que se ha significado por la ausencia de reformas de calado y también por el portazo a debates importantes que están en la calle

no solo la credibilidad de la clase política sino también de esta misma institución como referente para resolver los problemas de los vascos

enredado en debates de políticos para políticos decía usted

que también aquí se puede hablar de la rgi sin censuras aquí se puede hablar de lo que la gente habla en la calle

y que por tanto pueda haber una verdadera participación del conjunto de los vascos en la decisión política yo me comprometo a traer a esta institución los debates que están en la calle los que preocupan verdaderamente ya hemos

y mi obligación y lo sé y la de mi grupo es actuar de manera constructiva responsable y crítica pero espolear la acción de un gobierno que se adormece

euskadi necesita ambición para generar un tejido productivo capaz de retener y atraer el talento en una de las sociedades más envejecidas de europa

el dinamismo económico es la premisa indispensable para responder con decisión a los retos

hablaba usted en términos que son gratos a mi formación política cuando dice que la creación de empleo es la mejor política social y que el crecimiento económico es la base de cualquier política social posible

nuestros problemas están ahí crecimiento demográfico negativo

pero se traduce en nuevas demandas socio sanitarias que es preciso poder atender una población activa cada vez más reducida que tiene que sufragar un sistema deficitario en euskadi la fuga de muchos de nuestros jóvenes a otros lugares que son más atractivos profesionalmente o una inmigración que tiene dificultades para su integración social y laboral algunos usted los reconocía en su diagnóstico por tanto hace falta una acción decidida para afrontar estos temas estos

de forma urgente con valentía sin querer mirar a otro lado y sin incurrir tampoco en el vicio de la legislatura pasada donde

en los debates donde se hablaba y se criticaba la gestión del gobierno de españa que

eso este parlamento está para controlar al gobierno y el gobierno está para dar cuentas a este parlamento

y arrojarle la culpa de toda mi incapacidad para llevar adelante mis proyectos de gobierno decía que hay algunos debates importantes que tienen que llegar aquí

hay un clamor para que llegue a las personas que realmente lo necesitan y se eliminen las situaciones de abusos y de fraude y que se garantice la sostenibilidad del modelo sabe usted lo sabe todo el mundo y todo el mundo lo reconoce

no solo en este aspecto sino también como servicio vasco de colocación encargado de la intermediación laboral en euskadi y que la tasa de intermediación que ha alcanzado apenas supera el tres por ciento está muy por debajo del objetivo marcado por el propio gobierno vasco

debemos emprender una reflexión integral que fije como objetivo darle la vuelta a los problemas estructurales de nuestra sociedad con medidas decididas que fomenten abiertamente la natalidad y el apoyo a la familia o que apuesten por una política social

promuevan de manera firme la integración socio laboral señorías desde el pp estamos convencidos de que solo sumando euskadi y el conjunto de la sociedad vasca encontrará un camino de progreso estable y duradero

que genera estabilidad y confianza nuestro proyecto apuesta por una sociedad abierta en la que los vascos vivan con naturalidad su identidad

entre ser vascos o españoles una opción que se contrapone a un modelo de construcción soberanista que en nuestra opinión supondría un retroceso

empobrecimiento y un paso atrás en nuestra convivencia esta visión soberanista a la catalana de quien dice que siente envidia

esta mañana en la tribuna la señora iriarte que por cierto

de mayores aproximaciones en esta cámara yo no puedo estar más lejos del pensamiento de eh bildu ni de la señora

me ha gustado sinceramente la importancia que ha dado en su intervención y que la empezara así

la denuncia que ha hecho de la situación minorizada que padecen en una sociedad como la nuestra que se dice avanzada estoy profundamente en que la violencia contra las mujeres es consecuencia de una desigualdad de fondo

preocupar y constituir verdaderamente una prioridad nosotros estaremos ahí y estoy también con usted en que el siglo veintiuno tiene que ser definitivamente el tiempo de las mujeres y de su promoción real hasta aquí las coincidencias ya a partir de ahí me resulta

yo no puedo aceptar que se presente como la referencia

que si no está en estos escaños es como consecuencia de haber sido condenado por formar parte de una organización terrorista qué injusticia señora iriarte lo verdaderamente injusto

a condenar a eta y promoviendo activamente su legitimación por lo demás señora iriarte su discurso ha sido me lo permitirá no se sienta ofendida pero es los calificativos que a uno se le ocurren tratando de suavizar el discurso

autarquía energética supongo que poniendo placas en los tejados

autarquía energética utopía fiscal porque encuentra usted dinero para todo

sueldos subvencionados e incluso soberanía alimentaria para terminar con la obesidad porque debe ser que nuestros productos no engordan sea lo que sea lo que uno coma

semejante proyecto pero comprenderá que nos sentimos un tanto interpelados y no lo voy a poder apoyar comprenderá que ni le voy a apoyar hoy

señorías así están las cosas y esto es lo que los riesgos que nosotros vemos

las posibilidades que aquí se abren y la ruta que fija ese papel

esta no lo sé yo solo le quiero decir una cosa tiene usted una alternativa y tiene usted y su y la coalición que representan no tienen mayoría

el partido popular y si usted va por ese camino puede contar con nuestro ánimo de colaboración y de encuentro pero no piense que puede utilizar tampoco los votos de este grupo

o nuestro discurso político solamente para aquello que no le quiera sacar adelante el grupo de bildu no piense que nosotros vamos a poder sostener un gobierno

quebrar la convivencia de los vascos porque nosotros somos en esta cámara la única alternativa al proyecto nacionalista en el país vasco y queremos serlo con la mano tendida para el diálogo yo llevo diciendo esto desde que fui nombrado

en este debate en el parlamento vasco pero lo seguiremos haciendo

nuestros marcos de referencia nuestros marcos de convivencia y siempre que ustedes no busquen la mayoría en la fuerza más radical

necesidad a ver si esta legislatura de verdad señorías damos un salto cualitativo sobre la etapa anterior con ambición para recuperar el liderazgo para que sea verdad todo eso que dice

lo dice en un tono del principio de responsabilidad al principio

de legalidad si su gobierno sigue esas prioridades de moderación y de estabilidad sepan que el partido popular estará siempre apoyando todos aquellos esos proyectos que sean positivos y que sirvan de verdad para mejorar

señor alonso la verdad es que con su tremendismo

lo habrán espabilado pero venimos a la arena política y hoy venimos a este pleno a decidir si alguno de los dos candidatos merece la confianza de esta cámara para ser lehendakari no es un proceso de investidura de liderazgo de la oposición es un proceso de investidura para quien quiera dirigir este país en los próximos cuatro años y los socialistas vascos venimos a esta sesión

las líneas por las que debe discurrir este país en los próximos cuatro años y nos sentimos orgullosos del trabajo realizado etorkizunerako proposamen bat

esta mañana si los socialistas no hubiéramos alcanzado un acuerdo con el partido nacionalista vasco si el partido nacionalista vasco hubiera optado por gobernar en solitario eh bildu renunciaba a este protagonismo que le concede hoy el reglamento de esta cámara

que realmente está sobre la mesa de esta sesión de hoy la que hemos tejido entre partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi con mucho diálogo con muchas dificultades

de buscar lo que pudiera unir a dos partidos muy diferentes porque han sido siete semanas muy intensas en contra de lo que se hubiera dicho nada estaba escrito de antemano nada todos acudíamos con nuestras manos absolutamente libres para tomar

y mientras otros escenificaban secuencias de aparente diálogo de las que no salían ni un solo acuerdo los socialistas hemos consensuado con el partido nacionalista vasco

sobre todo mirando a todos los retos del futuro porque no hemos cerrado un acuerdo pensando en cómo transitar estos cuatro años sino en cómo cimentamos

para quienes nos siguen puedan seguir contando con una sanidad y una educación públicas una protección social que no abandone a nadie una economía que genere

y oportunidades para quien hoy no las tiene unas herramientas de autogobierno que hagan eso posible y unas bases éticas sobre las que construir la convivencia creemos que la pasada legislatura pusimos las bases para que este acuerdo

los socialistas trabajamos con mucha intensidad los pasados cuatro años para que al menos no se diesen pasos atrás irreversibles en nuestro sistema de servicios públicos

con el resto de la oposición en otros para ampliar aún más esos derechos para paliar daños que nos venían de decisiones ajenas a nuestra voluntad pero considerábamos y así se nos ha escuchado de forma reiterada en esta tribuna y fuera de ella que había que empezar también

que había que pensar en las próximas generaciones el resultado probablemente no satisface de manera plena a ninguno de los dos partidos pero lo que se presenta en esta sesión es un acuerdo pero tenemos también de la realidad nuestras propuestas no saldrían adelante con solo nueve escaños de setenta y cinco se ha apuntado estos días que este acuerdo es insuficiente porque no suma la mayoría absoluta de esta cámara yo creo que sí es suficiente lo creo porque la historia de euskadi lo avala fueron gobiernos en minoría los de las dos primeras legislaturas que encabezó el lehendakari garaikoetxea durante los seis primeros años fueron gobiernos en minoría a pesar de sumar una coalición de tres partidos

el lehendakari ibarretxe durante diez años más fueron gobiernos en minoría aunque con un apoyo externo para determinadas políticas

con todos estos precedentes diremos que la mayor parte de la historia democrática de este país ha estado dirigida por gobiernos que en su composición

es más llegó a haber un gobierno de coalición con mayoría absoluta

el problema no es que este sea un pacto que algunos de ustedes se empeñan en llamar cojo la cuestión es si quienes lo respaldamos somos capaces de trabajarnos

del resto de grupos de la cámara para tejer espacios de acuerdo pero también si los grupos están por la labor de aportar ideas y sumar esfuerzos objetivos compartidos porque en eso consiste el parlamentarismo es curioso que algunos hablen de debilidad por cuestiones numéricas los mismos que hacen esa acusación comparten con nosotros la denuncia del abuso de la mayoría absoluta

así que pierdan miedo señoras y señores parlamentarios aquí no hay riesgo de rodillo de lo que hay riesgo por el contrario es de que haya propuestas de mero bloqueo porque coincidencias desde la oposición puede haberlas de forma puntual entre tres fuerzas tan dispares pero estoy convencida de que pasado este debate y desde la legitimidad de sus iniciativas intentarán utilizar sus respectivas fuerzas en lo que más interesa realmente a los ciudadanos no en lo que le rente en las próximas elecciones desde luego los socialistas defendemos la necesidad de dialogar con el resto siempre y para nosotros

de país la mejora del autogobierno y la convivencia sí pero son

el empleo la plena incorporación de la mujer a la economía el reforzamiento de los servicios públicos las nuevas atenciones que requiere el envejecimiento de nuestra sociedad

la preparación de nuestros jóvenes la extensión del derecho a la vivienda las medidas contra el cambio climático todas esas son piezas de un mismo puzle que conforman

y no nacionalistas todos debemos partir de nuestra realidad de la que representan los escaños con los que contamos y también con los que no contamos desde esa realidad

y oposición desde la realidad de que nadie podemos abordar esas políticas con nuestras solas ideas por muy buenas que nos parezcan o nos sigan pareciendo

que nos va a permitir otorgar nuestra confianza al candidato que propone el partido nacionalista vasco

trabajada es conocido que a pesar de haber pactado una serie de políticas la pasada legislatura mi grupo expresó dudas sobre la gestión del gobierno anterior

los socialistas asumimos el compromiso añadido de compartir las responsabilidades de gobierno eso exige por parte de ambas formaciones un esfuerzo suplementario de lealtad pero es también una garantía añadida de que el proyecto defendido esta mañana

va a llevarse a cabo por eso vamos a ofrecerle esa confianza porque al dársela los socialistas vascos vamos a responder al compromiso adquirido ante los ciudadanos cuando nos presentamos a las elecciones todo lo que llevamos a las urnas el pasado veinticinco de septiembre sigue teniendo vigencia

compartir esos proyectos ofrecer bases más sólidas para poder llevarlos adelante y seguir abiertos a ampliar acuerdos en esta cámara con propuestas de otros grupos

el puerto de llegada dentro de cuatro años debe ser un país

metido de lleno en el siglo veintiuno y con ciudadanas y ciudadanos protegidos desde los principios de la igualdad la solidaridad y la justicia social nuestro voto de hoy

un voto coherente con lo que los socialistas nos comprometimos durante la campaña electoral porque nuestro compromiso y nuestra lealtad es con los ciudadanos a los vascos y las vascas les dijimos que no había nada más urgente que recuperar la economía

y el primer objetivo que nos hemos fijado la primera acción política el primer plazo que nos ponemos para esta legislatura es diseñar e impulsar un nuevo plan de empleo

la economía a base de cifras se trata de recuperar a quienes más han sufrido durante la crisis a los trabajadores y a las trabajadoras

más afectadas por el cierre de empresas a ellos y a ellas se dirige este acuerdo

durante la legislatura con planes para la margen izquierda la zona minera

o en encartaciones también se dirige el acuerdo a quienes tienen

y compromiso con el país porque son imprescindibles en este proceso de recuperación y se dirige a todos los trabajadores y trabajadoras porque hay propuestas que no solo se fijan retos para disminuir la tasa de paro sino para favorecer el empleo de calidad para hacerlo

para aumentar la inspección y evitar riesgos laborales y para impedir los fraudes en la contratación para extender las cláusulas sociales en la contratación pública este es un pacto para utilizar hasta la última de nuestras competencias para transformar la economía para recuperar derechos sociales

a la mujer de forma plena en la actividad económica porque para nosotros esta era una cuestión

la de la mujer en pie de igualdad real en la hoja de ruta que nos hemos marcado para esta legislatura las mujeres dejan de estar en un capítulo aparte en el capítulo de la protección social hoy hay como no puede ser de otra manera un compromiso expreso y reconocido en la lucha integral contra la violencia de género pero en este acuerdo la plena participación de la mujer en todos los ámbitos sociales empezando por el económico pasa a ser un principio que atraviesa

sus peores condiciones laborales la enorme brecha salarial son la causa de su especial vulnerabilidad social y en vez de buscar solo parches queremos actuar

además de por justicia hemos decidido aprovechar en este nuevo impulso económico todo ese capital humano todo ese potencial y hacerlo así obligará a abordar otras políticas en el ámbito social y en el de la conciliación que pasan a ser cuestión de todos y ya no solo

legean en esa transformación pendiente también nos proponemos recuperar el pulso de la apuesta decidida por la investigación y la innovación en la peor de la situación de las arcas públicas los socialistas estuvimos convencidos de que incrementar esa inversión era una política anti cíclica imprescindible para afrontar una mejor salida de la crisis la pasada legislatura los socialistas impulsamos un gran pacto en esta cámara

para aumentar cada año el presupuesto en esta materia ese pacto queda blindado ahora como compromiso del futuro gobierno entendemos que los grupos que compartieron entonces los objetivos que planteamos los socialistas ahora también seguirán defendiendo esa apuesta crear empleo innovador y de calidad sí

que llevan más de dos años buscando trabajo y no lo encuentran

les alivia en su día a día pero solo como un parche a quienes se sienten condenados a depender de esas ayudas ahora y cuando empiecen a acceder a la jubilación a ellos y a ellas también se dirige este acuerdo apostamos por formarles con intensidad ofrecerles un itinerario personal profesional

sus vidas los socialistas creemos que es un objetivo que no solo les ayuda a salir de la dependencia sino a recuperar en la sociedad tenemos un instrumento para hacerlo que es lanbide y asumimos como compromiso de gobierno lo que acordamos ya hace dos años reformar lanbide hacerlo útil y hacerlo con los agentes sociales y económicos porque el objetivo de nuestra protección social es que cada vez haya menos gente que necesite de la renta de garantía de ingresos y también hace falta ahí

pero una reforma para atender a las nuevas realidades sociales que se han presentado y que por distintas razones están quedando excluidas sobre esto también teníamos una base compartida todos los grupos de esta cámara excepto quienes se empeñaron el debate aquí ya había una mayoría y espero que siga siendo tan amplia como era antes

nuestro modelo de protección que defendemos que la renta de garantía de ingresos debe llegar a todo el que lo necesite para sortear baches de la vida y no para condenarse de por vida y que rechazamos cualquier tipo de fraude que nadie se quede sin un euro de los ciudadanos que no le corresponda pero que nadie a quien le corresponda

esa va a ser la propuesta a compartir también nos trabajamos una mayoría de esta cámara para hacer la ley de vivienda más ambiciosa de españa

que más allá de los varios cientos de familias que han accedido a una vivienda de la que nos disponían hasta ese momento un recorrido a medio plazo superadas las desconfianzas el futuro gobierno desarrollará ese derecho subjetivo en los términos en los que lo aprobamos aquí hace apenas medio año sin recortes sin establecer más requisitos de los que se exigen para otras ayudas creo que es otra de esas políticas en la que nos vamos a encontrar una mayoría aún más amplia de la que aprobó la ley en su momento

a compromiso de gobierno lo que los socialistas habíamos conseguido como compromiso presupuestario impedir

que nadie en este país se quede sin suministro de agua electricidad o gas por no poder pagar las facturas en este año hay mil trescientos familias que han sido atendidas gracias

pero hablamos de una cuestión que va más allá de las ayudas hay que proteger al consumidor vulnerable y en esta tarea hay cuestiones que exceden de nuestras competencias

también creo que es una preocupación ampliamente compartida en esta cámara y en la que seguro que nos encontraremos espero que todos lo hagamos con los pies en la tierra porque solo poniendo los pies en la tierra ese millar de familias ha tenido una respuesta

kanpo gelditu unas políticas públicas que son posibles gracias a decenas de miles de empleados que prestan sus servicios a los ciudadanos son andereños maestros médicos enfermeros y enfermeras son ertzainas son quienes atienden a quienes requieren las ayudas sociales

a ellos y a ellas se dirige también este acuerdo que compromete al gobierno en la consolidación de esos puestos y en planes de reducción de la interinidad y del relevo generacional

quienes van a hacer posible la garantía pública del derecho a la salud la garantía pública a una educación que busca la excelencia y la equidad y por eso queremos implicarles en la gestión de esos servicios para que puedan atender mejor a sus pacientes para que tengan apoyo con los escolares que tengan dificultades porque lo público

queda expresamente avalado en la hoja de ruta que debe seguir el gobierno

los socialistas no vamos a prometer aquello que no estamos en condiciones de garantizar pero a la vez el rigor presupuestario no va a poner en riesgo nuestros servicios públicos

en un debate monográfico hace dos años y también lo elevamos a compromiso de gobierno vamos a reforzar junto a las diputaciones la lucha contra el fraude fiscal y esta cámara será la que debata y apruebe cualquier modificación de los criterios que permitan una política tributaria homogénea que profundice en la progresividad y la equidad y que permita obtener más recursos para seguir haciendo viable nuestro modelo social

sin dañar más a las familias he citado cuestiones en las que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi hemos mantenido diferencias unas más sonoras que otras a lo largo de la pasada legislatura cuestiones en las que los socialistas hemos sabido ir buscando consensos

cuestiones que ahora hemos incorporado como líneas de actuación del gobierno y deberíamos de seguir trabajando con la oposición por nosotros no va a haber problema al contrario hemos demostrado que somos un cauce adecuado para transformar las propuestas

y somos conscientes también de que los vascos y las vascas coinciden ampliamente en la necesidad de actualizar nuestro autogobierno no es una de sus urgencias no lo es

las que sí urgen a los ciudadanos el empleo la reactivación económica y los derechos sociales y compartimos sin complejos con los nacionalistas que existen posibilidades de mejorar esas herramientas

ha sido un éxito un motor fundamental para el progreso de euskadi o como compartimos que ese progreso se ve mermado por el bloqueo sistemático que el último gobierno de españa ha realizado ante cada iniciativa que se ha impulsado en el ejercicio de nuestras competencias

al repago que luego hemos conseguido compensar el intento de bloquear la expansión del derecho a la vivienda o la limitación del fracking o completar la plantilla de la ertzaintza o reparar a quienes han sufrido

arazo berriak sortu por eso hemos acordado continuar los trabajos iniciados en la pasada legislatura hay una formación nueva

las de los demás ya las conocemos las nuestras están depositadas desde enero de este año en el registro de esta cámara y los socialistas lo reprodujimos en nuestro programa electoral queremos reforzar nuestros derechos sociales para hacer del autogobierno un instrumento más útil a la ciudadanía eso requiere establecer cauces seguros para actuar

por recursos de cualquier otra instancia reconocemos las diferentes formas de sentirnos vascos que tenemos todos y entendemos que así debería reflejarse también en esa actualización y el resultado del trabajo debe ser fruto de un amplio consenso entre diferentes y respetando los procedimientos establecidos

y el resultado dentro de las limitaciones de la guerra civil y del exilio fue de éxito de colaboración entre diferentes

la etapa de mayor progreso de euskadi y así deberá ser en lo que seamos capaces de acordar consenso y trabajo y respeto a los procedimientos establecidos es el método que planteamos para abordar esa tarea pendiente en la que nos comprometemos es el acuerdo que dio lugar a la ponencia en la pasada legislatura y a partir de ahí todos los grupos

de todo los socialistas vamos a seguir proponiendo una reforma constitucional creemos que tendríamos mucho más margen de autogobierno pero como ya dejamos escrito en enero

con los límites que todos previamente debemos reconocer para lo que no tenemos límites externos es para tratar también de otra tarea inconclusa la de reformar

hacía dentro mejorar el ordenamiento de todos los niveles institucionales con el único objetivo de ser más eficaces en la resolución de los problemas de los ciudadanos vascos

creemos que las políticas de la construcción de la convivencia deben ser compartidas por todos los grupos y nos consta que hay una gran mayoría que considera que hay un paso previo e imprescindible que es la disolución

a partir de esa exigencia que hacíamos en el pasado y que mantenemos hoy los socialistas hemos hecho un especial esfuerzo en los últimos tiempos en gobierno y en oposición

que ya conocemos cuando tratamos algo tan sensible hemos comenzado este pleno

recordando a un parlamentario que le asesinaron por defender unas ideas

no debió ser asesinado que no hubo razón política ni razón de estado que pudiera justificar ese crimen eso que hemos pensado en silencio deberíamos de poder decirlo en voz alta

de cada asesinato debemos decirlo en cada secuestro cada amenaza cada vulneración de derechos que ha provocado eta o con la excusa de la existencia de eta por los gal por el batallón vasco español por la triple a o por la ate

o por cada torturado víctimas iguales en sufrimiento pero distintas en sus causas pero todas igual de injustas si todos lo compartimos

a construir la convivencia si todos asumimos esa realidad del pasado podremos empezar a construir un futuro mejor eso es lo que nos hemos propuesto los socialistas cuando hemos suscrito el acuerdo por el que vamos a dar nuestra confianza

mirar al futuro y empezar a enderezar el país sobre bases sólidas

mirando en cada folio del acuerdo a los ciudadanos de este país a las mujeres a los trabajadores y trabajadoras a los mayores a los abuelos a los nietos a quienes buscan empleo y lo hacemos sin complejos mojándonos ofreciendo derechos sociales consensos y legalidad porque es lo que hemos hecho siempre es lo mejor que hemos sabido hacer y es cuando mejor les ha ido a los vascos siempre

cada escaño que nos concedieran se iba a volcar en ofrecerles respuestas y no presentarles problemas nos comprometimos a ofrecer estabilidad y certidumbre

con los que piensan diferente para construir un país juntos

tenga también reflejo en las políticas que salen de esta cámara eso es lo que hemos hecho y no nos duelen prendas

se pacta siempre con quien piensa diferente no con quien piensa igual que tú y en este país de gentes tan diferentes en sentimientos e ideas los vascos y las vascas necesitamos

ni el pnv se ha hecho socialista ni el partido socialista de euskadi se ha hecho nacionalista

nos hemos comprometido con soluciones para los ciudadanos nacionalistas y no nacionalistas y nos encontraremos con otros grupos nacionalistas y no nacionalistas

comenzamos una nueva etapa con el mismo objetivo conseguir que ciudadanos diferentes que se sienten vascos y vascas de forma distinta tengan garantizado por igual el derecho a tener un proyecto de vida digno el cualquier lugar de esta comunidad compartida que es euskadi

boterezko politika kontinuistan un acuerdo en el que todos estos imposibles se hacen posibles para que otras posibilidades una mayoría progresista sean imposibles hitzarmenezko

koalizioaren ikuspuntua el día de hoy

es nuestro primer debate de investidura el primero de los debates que vamos a tener en esta

algunos expertos dijeron que no llegaríamos nunca dijeron que la política vasca no era cosa nuestra que euskadi era ajena a lo que decíamos

hoy se evidencia que se equivocaban no solo porque aquí estamos sino porque estamos con una fuerza considerable a este parlamento hemos venido para hablar de euskadi y para poner encima de la mesa diferentes modelos de sociedad

también de formas distintas de hacer política y en este juego a tres

con quién ni por qué la ciudadanía ha quedado como un convidado de piedra sus necesidades sus urgencias sus anhelos han pasado otra vez a un segundo plano una vez más lo más importante la gente

son las exiliadas de la política y precisamente por ello yo quiero hablar de todas aquellas que faltan que faltamos en ese acuerdo las que faltamos porque no tenemos empleo mayores de cuarenta y cinco años

y queremos concreción acciones y no buenas palabras las jóvenes que nos fuimos de euskadi porque no encontrábamos empleo esas a las que algunos animaban a irse

las que faltamos porque tenemos un empleo precario porque a pesar de tener un empleo no dejamos de estar en riesgo de pobreza

o no llegamos ni al principio por las muertas por frio por la pobreza por la miseria y por la precariedad es necesario tomar medidas para que no sigamos siendo las últimas las olvidadas las que no tenemos voz ni para defendernos

y nos criminalizan todas aquellas a las que lanbide pierde nuestro expediente o nos piden documentación abusiva que vulnera nuestro derecho a la intimidad

hablan de reformar lanbide obviando esta cruel urgencia las que ni tan siquiera cobramos la rgi

además del tristemente famoso recorte del siete por ciento del que no hay ni rastro en este acuerdo de gobierno las que somos usuarias de servicios sociales por diversos motivos y nos marean de ventanilla en ventanilla

las mujeres que no podemos conciliar las mujeres que cobramos menos o tenemos peores trabajos las mujeres que volvemos a casa con miedo a las noches nosotras cuando salimos a la calle queremos ser libres y no valientes

y congelaciones de presupuesto en la lucha contra la violencia machista las personas inmigrantes que nos vemos criminalizadas y estigmatizadas

como moneda de cambio sacando rédito político al racismo de un modo más directo o encubierto

las personas inmigrantes que somos objeto de delitos de odio no queremos solo campañas queremos una norma contra los delitos de odio las personas lgtbq

y que seguimos sufriendo discriminación en las calles en los colegios y en el trabajo también agresiones

dan licencias por doquier para la implantación de centros comerciales y luego se olvidan de cuáles son las condiciones laborales de la mayoría de los jóvenes que trabajan allí las personas trabajadoras que operamos en las obras y servicios de contratación pública en las subcontratas

cuando tienen sociedades en paraísos fiscales esa cláusula de carácter social que regula la ley tres barra dos mil dieciséis

la administración podrá introducir cláusulas de carácter social

esa amplia mayoría que cree que hay redes clientelares y que se escandaliza con las puertas giratorias

en condiciones precarias para ellas tampoco hay ninguna respuesta en su pacto

no sé por qué pero me suena a externalización de los servicios las personas pacientes en lista de espera cuando hablan de seguir manteniendo los estándares actuales los alumnos y las alumnas que están en colegios públicos con falta de mantenimiento

y seguimos sin leer fechas concretas en sus compromisos los universitarios y universitarias

o a esa comunidad educativa que asiste asustada

privada en igualdad de condiciones que la pública las víctimas de otras violencias que por periodo de fechas ni tan siquiera entrábamos en la ley de julio y que nos hemos encontrado un acuerdo de gobierno muy poco ambicioso al respecto

que empezamos un incipiente camino y que nos encontramos un acuerdo de gobierno

ni concreción sobre el trabajo realizado en ese ámbito además de las que faltamos como veníamos diciendo es importante recordar que nos toca afrontar retos de muchísimo calado retos que también faltan en el citado acuerdo de gobierno no hace falta ver la situación que se vive en otros lugares para saber que

con sus fortalezas y debilidades tiene retos decisivos por delante en primer lugar retos de tipo social euskadi hoy es más desigual que hace cuatro años

así lo señalan todos los estudios y así lo percibe la ciudadanía las personas jóvenes pero también los mayores de cincuenta y cinco años sobre todo las que trabajan

sienten en primera persona que en euskadi hay menos oportunidades que hace una década y esto no se resuelve comparándose con otros territorios o países lo vamos a tener que resolver nosotros y nosotras

a parte como representantes de la ciudadanía vasca tenemos el deber de defender las conquistas de la sociedad civil

han sufrido recortes y siguen presentando cinco años después problemas de gestión graves problemas que son consecuencia de las decisiones de los dos últimos gobiernos señor urkullu vamos a ponernos de acuerdo para modificar la gestión de la rgi para dotarla

está dispuesto a iniciar su segunda legislatura revirtiendo el recorte del siete por ciento que hizo su predecesor y deshaciendo los entuertos administrativos que ha generado la transferencia de lanbide

puede que nosotras estemos en la oposición esta legislatura pero vamos a estar siempre muy cerca de la gente

para saber qué nos pide y muy cerca de ustedes para recordárselo

y muchas más la necesitan hoy más que nunca para seguir avanzando y para construirse una oportunidad créame si le digo que nos están mirando

a quienes sufren el desempleo a quienes están precarizadas y mirarlas supone trabajar con responsabilidad en serio creen ustedes que decir que va a bajar el paro un tres por ciento y no decir cómo nos hace quedarnos tranquilas en serio creen que quienes miran

con desesperanza y acuden cada día a un servicio al que ustedes no mandarían a sus hijos e hijas pueden tragarse la promesa vacía

por otro lado esa bajada del desempleo que prometen es a costa de cualquier cosa la tasa de paro baja también con empleos

eso es lo que nos prometen nosotras creemos que para transformar el mercado laboral además de bajar el paro hay que apostar por otro modelo más sostenible más digno y uno que no nos deje atrás que no nos venda cuentos de hadas

y la coordinación institucional no existe y si existe

lo sé de primera mano es difícil hacerlo lo sé pero me gustaría creerles aporten ustedes concreción porque la ciudadanía

el modelo de sociedad que defiendo como mujer independiente y como parlamentaria de elkarrekin podemos

dicen algunos electos del parlamento vasco anterior que en euskadi las instituciones son a prueba de malas prácticas no cabe duda de que están mejor que en madrid pero tampoco eso tiene mucho mérito en este sentido

y deberemos seguir dando pasos más pasos y más avanzados

no se trata de pedir permiso para pasar a la empresa privada

simplemente son intolerables la ciudadanía vasca piensa mayoritariamente que hay clientelismo en euskadi es decir piensa que unas personas tienen

oportunidades que otras en función de su adscripción partidista el clientelismo

no lo olvidemos nunca no hablamos solamente de salud institucional que también

de situaciones de desigualdad de oportunidades que son bien conocidas por la mayoría de la ciudadanía vamos a abordar en serio en esta legislatura el caso de las puertas giratorias

la transparencia y la regeneración institucional son asuntos de país

ni sacar pecho ni esquivar las preguntas incómodas simplemente responsabilidad yo misma no voy a estar aquí para siempre

y no hay nada más razonable y sano que las personas que nos dedicamos a la política

y después vayamos a los lugares que nos correspondan o a los que podamos ir se trata simplemente de evitar que esos lugares sean consejos de administración

es tan sencillo como pelear por la separación entre el poder político y el poder económico

que la vida posterior de quienes tenemos cargos públicos no pasa por hacer o devolver favores una parte importante del bienestar de nuestra sociedad se juega en este ámbito que insisto tiene consecuencias sociales

muy relevantes para toda la ciudadanía hace cuatro años

defendió un gobierno de emergencia nacional con ocho consejerías

cuatro años después la sanidad y la educación siguen estando entre los principales problemas de la ciudadanía para nosotros y seguramente para todos los parlamentarios y parlamentarias que aquí estamos la salud es un derecho es un derecho humano individual y es un derecho colectivo que colabora en la eliminación de desigualdades

social de nuestra comunidad cuando un usuario va a un cajero de kutxabank antes de meter su tarjeta le aparece en pantalla publicidad de un potente seguro privado de salud es lógico ofrece en los tres territorios a sus empleados y a sus empleadas este seguro si usted trabaja en el ayuntamiento de bilbao como fijo o interino se le ofrecerá

de salud un sistema de salud mixto y más fragmentado de lo deseado esa es la situación de nuestro país los niveles de desigualdad

son especialmente alarmantes siendo peligrosos para la cohesión social del país situación desconocida en los últimos años con una preocupante tendencia a consolidar esta desigualdad en vez de corregirla sin duda

es fundamental para corregir esas desigualdades sabemos que son

y fundamentalmente la pobreza los responsables de las desigualdades pero un servicio sanitario fuerte bien financiado bien dimensionado en cuanto a sus recursos y bien organizado es parte de los determinantes mencionados

per cápita más alta de todas las comunidades autónomas del estado sin embargo consideramos necesario

crecer en al menos un uno por ciento del pib en su financiación a lo largo de esta legislatura

de acuerdo al inicio de la crisis teniendo en cuenta que hemos perdido

de todas las categorías en los últimos ocho años si hay más riqueza en nuestro país

y casi otro tres por ciento este año se debe redistribuir más y mejor las prioridades son las políticas sociales los países de nuestro entorno que disponen de políticas sociales bien financiadas han resistido mejor la crisis la actual situación social económica y demográfica en euskadi indica que habrá más personas vulnerables

viviendo más años en ocasiones en condiciones precarias con necesidad de mayores cuidados profesionales y sanitarios y también con mayores necesidades de protección social por todo ello proponemos un pacto de gobierno en defensa de la sanidad pública vasca y queremos que usted señor urkullu

como ven estamos aquí para hablar de euskadi y de sus acuerdos y para poner modelos de sociedad y de hacer política diferentes encima de la mesa los resultados electorales arrojan un mapa parlamentario inédito

hace apenas siete años hoy no llegan a la mitad de los escaños de entonces

en el que el acuerdo de gobierno que hoy trae el candidato urkullu por sí solo para gobernar en mayoría hablábamos de los retos que tenemos por delante que son muchos y de calado y después de una legislatura como la pasada en la que todos coincidíamos que fue una legislatura

la que empieza ahora tenemos que ser capaces de dar respuestas urteak eta urteak

eta ez blokeatzeko horretarako etorri nintzen behintzat por eso se lo repito nos gusta que su futuro gobierno sume solo treinta y siete porque esa minoría significa que el parlamento va a ser decisivo

mucho más para llegar a acuerdos sí pero para que tengan que escuchar todo el tiempo también este parlamento vasco va a ser relevante además

en la oposición y otros en el gobierno y el legado de esa mayoría por más que no lo sea de gobierno debe ser un legado de avance social y democrático eh bildu y pse y nosotros tenemos esa responsabilidad

a cómo podemos llegar a acuerdos que den respuesta a los retos que tenemos como nación la ciudadanía vasca ha abierto una nueva etapa y en esa nueva etapa todas las fuerzas políticas

todas vamos a ser necesarias y todas tenemos el deber de traer a esta cámara las necesidades anhelos y dolores de la ciudadanía a veces para discrepar otras para llegar a acuerdos pero siempre con el objetivo de que este parlamento vasco sea más útil que el anterior y los acuerdos de esta legislatura

que nos permita implementar aquellas políticas de avance social a nuestra ciudadanía sentirse orgulloso de su país de sus servicios de su sistema público y que podamos sumar al pse ahora que estas dos fuerzas con las que contamos para formar

vuelven a sentarse en la misma mesa para hablar de una agenda social alternativa

un acuerdo por la paz y la convivencia en nuestro país que esté

admitimos que con el pnv podemos llegar a muchos acuerdos en esta materia y estamos dispuestas

en este ámbito siempre y cuando se trabaje en base a la lealtad mutua y se tome activamente en cuenta nuestra opinión y por supuesto la de todos los demás

por último es notorio que una de las cuestiones centrales de esta legislatura

para elkarrekin podemos el autogobierno es la mejor herramienta de la que euskadi puede disponer para el blindaje de sus derechos sociales y esa es la concepción que nos diferencia del pnv lo hemos dicho por activa y por pasiva que nosotros a favor del derecho a decidir de la ciudadanía pero no solamente en el modelo de país sino también sobre los servicios públicos sobre los derechos sociales o sobre fiscalidad con qué herramientas participativas con verdadera capacidad de decisión

creo que ninguna pero también somos conscientes de que en este parlamento existe una amplia mayoría dispuesta a compartir como mínimo

más democrático y para decidir su futuro nuestra apuesta es la bilateralidad y la de los acuerdos enmarcados en la legalidad apostamos por la creación

mediante la participación no solo de los partidos políticos sino de los agentes sociales y de su ciudadanía apostamos por la creación

de participación y por supuesto de refrendo necesarios para recorrer este camino podemos llegar a acuerdos y estamos dispuestos a intentarlo las mayorías han cambiado no solo en euskadi también en madrid creo

pero también hemos mostrado una clara vocación a llegar a acuerdos y hemos señalado una serie de materias ahora la responsabilidad de permitir la circulación

ez da ez eraginkorra ez egonkorra izango este gobierno no será eficiente ni estable no será eficiente a la hora de resolver las necesidades que tiene el país porque está basado en los principiosde la política de siempre la de antaño

ofrecer caminos nuevos soluciones nuevas que nos puedan sacar del estancamiento su único objetivo es que quienes conforman ese gobierno sigan en eso

no será un gobierno estable porque será un gobierno en minoría podría haber sido un gobierno con el ochenta por ciento de esta cámara pero han decidido que sea un gobierno de mitad menos uno tampoco será un gobierno plural porque deja fuera

y si el gobierno no será ni eficiente ni estable ni plural no cumplirá con ninguna de las cosas que promete ser la pregunta es

qué mejoramos qué gana la ciudadanía con este tipo de acuerdos esta sociedad ha dicho que quería un acuerdo de país

que regular unas competencias mínimas y consiguió un sistema de poderes consiguió una aplicación de máximos y convirtió una región autonómica en un estado casi soberano por desgracia este acuerdo que nos ponen sobre la mesa

pasamos de plantear un estado a ser una región en el estado español y además una región que no avanza decía usted al final de su discurso comprometo estos principios desde dos premisas básicas

y ya le digo yo que puede comprometerse a esto porque no promete nada nuevo

y también yo le puedo garantizar dónde se va a encontrar este pueblo dentro de cuatro años exactamente donde estaba y esto es cada vez más lejos

y cada vez más cerca de españa y se lo ha dicho el señor alonso le ponía datos comparándolos con españa él lo decía con enorme satisfacción yo le observo con enorme preocupación y es verdad

es el momento de salir de la rotonda hay que afrontar los debates pendientes y hay que solucionar los problemas del pasado hace falta responsabilidad altura política y valentía

económica sabe usted lo que hacen los países avanzados no esperan no trabajan planifican y consolidan porque sabe usted lo que hacen los del final de la cola no esto porque al final todos ya sabemos que la teoría de la marea

no nos va ir bien a todos zure hitzak ere izan dira

cómo cómo si incluso las perspectivas iniciales de recaudación del dos mil dieciséis no se van a cumplir si la fecha del catorce de octubre del consejo vasco de finanzas ya

y cuatrocientos setenta y tres millónes de euros de recaudación dan para muchas cosas dan

y es cierto que el consejero de hacienda afirmaba que rajoy no pasaba nada porque rajoy iba a permitir endeudarse aún más a las comunidades autónomas

de euros tiene algo de positivo van a ser más deuda y van a ser también más recortes aunque los llamen inejecuciones presupuestarias pero son recortes

que une todas las condiciones para estar entre los países más avanzados

tenemos una presión fiscal del treinta coma noventa por ciento del pib en dos mil catorce mientras que la media europea es del cuarenta la de la zona euro del cuarenta y uno coma cincuenta el de francia de cuarenta y siete coma cincuenta

y además esto lo recaudamos de una forma absolutamente injusta porque más del ochenta y cinco por ciento de la recaudación de impuestos directos

por lo cual las rentas de trabajo reciben una presión injusta y decía

no tiene sentido que los inversores por no hablar de los especuladores tengan que pagar menos impuestos que quien trabajo duro para ganarse la vida es lo que hace este sistema impositivo nosotros como país estamos dispuestos a dar ese paso queremos ser un país avanzado eta aipatu duzu sektore industriala ere

pero también es cierto que para eso en los años ochenta este gobierno vasco activó una política industrial

como la aeronáutica la energía pero no ha habido una actualización realista de esas políticas si en dos mil siete antes de la entrada del gobierno del psoe y posteriormente de su gobierno el peso del pib de la industria era del veinticinco coma seis el dato para el dos mil catorce nos sitúa en el veintiuno coma dos ciento setenta mil puestos de trabajos perdidos y seis mil empresas cerradas a pesar de que tenemos a la juventud vasca más preparada

de treinta a treinta y cinco años tienen titulaciones superiores este es el balance en dos legislaturas porque en política industrial es donde más se nota la mentalidad de silo

donde se encuentran los diferentes niveles de gobernanza divididos y donde se han sacrificado

porque veamos también la propuesta basque country cuatro punto cero que se inspira en la alemana de industria cuatro punto cero de cuándo es la propuesta alemana desde el dos mil seis

la copia que estamos realizando no solo va perdiendo por el camino millónes de euros va perdiendo diagnóstico va perdiendo principios inspiradores como son el foro de discusión

qué está ofertando a las pequeñas y medianas empresas este aquí es necesario un planteamiento de liderazgo público y aquí tenemos un problema porque ustedes no están con las empresas no hablo del lobby patronal hablo de las empresas

y me pedía como profesional del sector que trabaje para fortalecerlo si no también no hablamos de la valoración del plan de industrialización dos mil catorce dos mil dieciséis pactado por el partido socialista y por el pnv zein da emaitza zerbitzu aurreratuetan ez dago

baloratzen dutenean esaten dutela ezinbestekoa dela estrategia gauzatzea herri bezala y eso es entre todos y todas y ahí estamos dispuestos porque en política industrial el gobierno vasco se parece a las empresas familiares aquellas que fundan los abuelos

y en esa fase estamos tenemos los recursos humanos y materiales para poner en marcha política industrial la política industrial que necesita este país pero falta el liderazgo público

consensuada con todos los agentes políticos sociales y económicos que revierta desde luego las privatizaciones y que atienda la necesidad urgente de transformación ecológica de la economía y de la sociedad

y diversificado en cuanto a la especialización productiva desarrollar una política industrial requiere de inversión y dejar de lado desde luego

fomentar el gasto público para mejorar el tejido productivo y en paralelo también recuperar el control del empleo participando en las empresas privadas si se está invirtiendo en ellas y fomentar empresas públicas así como el sistema financiero de calidad apuestas interesantes que se han realizado en el pasado como la apuesta que se hizo por la fibra óptica

vendérselo a los amiguetes en lugar de eso hay que hacer apuestas de país

hacer apuestas de país al servicio de este país ese es el país avanzado y compartido que ofrece euskal herria bildu eta hori da planteatzen dieguna ere zuekin garatzeko

pero tampoco aquí he visto la autocrítica mientras que desde europa sí se hace una crítica y se dice

a su vez en tecnología aquí décimos que estamos en la excelencia sin embargo la inversión cada vez es más baja

al uno coma ochenta y cuatro por ciento del dos mil quince y falta la autocrítica

que aumentemos las dotaciones presupuestarias si no sabemos en qué gastar no nos va a hacer más eficientes tampoco en investigación y en desarrollo y la red vasca de ciencia y tecnología les ha aportado suficientes indicadores escuchen también las quejas de los investigadores lo que se dice sobre la burocratización en este oficio pero no es solo eso

la inversión pública tenemos que hacer también que la inversión privada suba y aumente eta gero daude pertsonak ikertzaileak ze guzti hori sostengatzen dutena pertsonak dira

politika propiorik igual igual en la política energética plantea una política energética competitiva y sostenible

no hay un planteamiento firme para hacerle frente no hay un planteamiento que incorpore redes de distribución inteligentes

la apuesta estratégica que ustedes hacen obvia la generación y la distribución

una estrategia a la que le faltan dos patas va a ser coja respecto a la creación de empleo también dicen que la industria genera empleo y la administración en estos momentos la mayor

también tenemos que fijarnos aquí un objetivo no mirando

no contentando al señor alonso tenemos que hacer una estrategia que mire a europa y aquí qué tenemos que la cantidad de empleos públicos corresponden al veintiuno por ciento esa es la media europea

además nos permitiría revertir todos los recortes en personal que se han hecho en sanidad

sectores claves para el bienestar del conjunto de la ciudadanía pero vamos en la dirección contraria vamos en la dirección contraria a un país avanzado justo

es muy preocupante y son los recortes lo que es de verdad preocupante y aún más doloroso porque no responde realmente a nuestra capacidad como país sino fundamentalmente a las restricciones

desde madrid proponemos revertir tendencias fortalecer el empleo público y restaurar la jornada laboral de treinta y cinco horas en la administración que tampoco es un invento nuestro no solo porque ya estaba sino porque es una medida que se aplica aunque sea con matices en países como holanda dinamarca noruega suecia alemania o suiza hay estudios y datos sobre su efectividad y efecto positivo

y es intolerable que el gobierno vasco en lugar de promover esto fomente la precariedad desde el sector público herri aurreratua

en gasto social sale caro sale muy caro y la valoración de la gestión de estos años también ha sido muy escasa

y qué les vamos a decir a todas esas personas porque no invertir sí que sale caro señor urkullu berdin jarraituko dugu edo egitera goaz gaur egun la protección social no llega a todas las personas que lo necesitan y aún menos a las personas más empobrecidas y precarizadas

y ya son casi quince mil los parados de larga duración que no reciben prestación alguna de que nunca se ha posibilitado a los jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro años a acceder a ella cuando es uno de los sectores más precarizados y más necesitados de estas ayudas ha explicado la señora iriarte nuestro planteamiento para las pensiones hay más de veinticinco mil jubilados que tienen que complementar con la rgi sus pensiones tenemos más de ciento sesenta mil que no llegan a los mil ochenta que planteamos eta

eta herri honek irailaren hogeita bostean sostengatu zuen ehuneko hirurogeita hamabostean erabakitze eskubidea prometió usted una consulta vinculante a este pueblo en dos mil quince y lo incumplió nos propone en su discurso una mirada de largo alcance

retrotraerse al planteamiento del lehendakari ibarretxe lo siento me equivoqué usted retrocede aún más y no precisamente a los tiempos de lehendakari agirre señor urkullu habla usted del respeto

en el estado español eso significa subordinación de los principios democráticos al ordenamiento jurídico va a aceptar que este país sea subalterno en el estado español

que se exilió precisamente por poner el principio de democracia por encima del de la legalidad impuesta por el gobierno

qué le queda a este pueblo y lo decía david fernández o hay una vía democrática a la independencia o habrá una vía independentista a la democracia

pero no nos engañemos no suspende porque no haya estudiado lo suficiente no le interesa aprobar determinadas materias no quiere aprobar en lo social no quiere aprobar con la mayoría sindical ni con el que más sufre eso

tramua da diez mil eta cuarenta mil euro bitarteko tramua

horrek ez nau harritzen me extraña más la omisión

de podemos y de bildu en este tema porque yo digo bueno como no somos nuevos en la materia pero

cada cual busca sus referencias me extraña que no haya citado ni podemos ni eh bildu los acuerdos que en esta materia por ejemplo hemos conseguido en navarra

si el paradigma del progresismo sois somos tenemos un acuerdo en navarra o no lo conocemos sobre la renta nueva renta

porque si la síntesis de navarra con las posibilidades existentes en la actualidad nos ha dado para alcanzar un acuerdo yo digo

vinculados a aquel acuerdo que valoramos positivamente pero aquí estamos mejor

y no voy a enumerar si alguien ha tenido el detalle de comparar o compararse pues podrán medir

dos detalles por lo menos para podemos que es de la semana pasada comisión de empleo

diputada de podemos a la hora de hablar de quién puede determinar el salario mínimo interprofesional reclamamos

que consultar sí pero decidir no decide el centro y la famosa ley veinticinco la de la emergencia social de la legislatura

la anterior alegando una invasión competencial reclama podemos para sí como competencia exclusiva la asistencia social

se votó acta doble pero por si cupiera alguna duda

este fin de semana he leído también el periódico y gara ha sido en euskera pero me ha parecido un debate muy interesante el que ha mantenido elena franco con juan carlos monedero eta

esaten duena la solución no es renunciar a la utopía

y de justicia social el pensamiento utópico que no acepta el hecho de que sin la realidad dada

nada tenemos y que desprecia la gradualidad de un buen gobierno porque lo que hay que hacer no son reformas sino revolución es la mejor manera de garantizar la permanente frustración por lo tanto el pnv ni resignación ni fatalismo creemos en la utopía como inspiración para hacer programas y acciones creíbles que sirvan para avanzar en parámetros de justicia social bakea eta bizikidetza

todas las menciones que usted ha hecho a lo que ha sido mi intervención de esta mañana y en cualquier caso también a lo que ha sido el acuerdo suscrito entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi además de tratarme como consejero delegado no he entendido muy bien porque usted me ha felicitado por el acuerdo pero al mismo tiempo ha dicho que no le gusta en cualquier caso

una intervención bastante ácida crítica para con el partido socialista de euskadi como era de esperar en lo que es su planteamiento reconocible de lo que es

del constitucionalismo ha hecho una interpretación del acuerdo ha hecho constantes reproches al partido socialista de euskadi pero me ha parecido curioso porque los ha hecho mirándome a mí

hemos echado de la mesa al partido popular que hemos excluido al partido popular

sí en cuanto a lo que ha dicho en defensa de la apuesta soberanista

a la nada dando por hecho que vamos a una desconexión legal pactada a fuego lento que es lo que usted ha venido a decir también yo creo que

al meter la mano en la redacción de lo que haya sido el acuerdo entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi sí creo que hay una cuestión que

donde usted confunde nuevamente de manera torticera interesada

porque usted hamezclado lo que es el planteamiento que yo hago del final ordenado y usted ha dicho ni ordenado ni negociado vuelve usted a lo que es un discurso

victoria o derrota ha planteado en orden a lo que es la voluntad de diálogo para una estabilidad política económica social también lo que es nuestra situación de minoría y la experiencia de la legislatura pasada en cuanto al calendario legislativo el programa legislativo

mire señor alonso sus compañeros y compañeras de bancada del partido popular le podrán reconocer aunque sea en voz baja y en privado le podrán reconocer que en la actitud en la actuación parlamentaria hay estrategias parlamentarias y que nosotros hemos conocido también las estrategias parlamentarias de una mayoría de la cámara frente a la minoría que representa

que habiendo presentado proyectos de ley ha habido proyectos de ley que han tardado en dilucidarse en esta cámara más de año y cuatro meses más de año y cuatro meses con estrategias parlamentarias también de dilación de lo que son los debates

no impute señor barrio que usted lo sabe perfectamente señor barrio a la inacción del gobierno en todo caso a mí no me gusta el modelo del partido popular que con una mayoría absoluta en el congreso de los diputados en la legislatura pasada ha promovido

cuantísimos decretos leyes decretos leyes que han sido aprobados

a lo que pudiera ser el debate en el congreso de los diputados en cualquier caso planteaba usted portazo a los debates que están en las calles creo que en relación a lo que es la iniciativa que por dos ocasiones creo que el partido popular trajo a esta cámara en relación a la renta de garantía de ingresos

o digan sus compañeros y compañeras si no hemos debatido en esta cámara las iniciativas que se han planteado y en todo caso

acepten lo que pueda ser una decisión de la mayoría en este parlamento ya entraré después en lo que pueda ser si me da el tiempo para las cuestiones de independencia unidad española o unión política etcétera o dentro de españa y dentro de europa en cualquier caso

ustedes se autoexcluyeron del diálogo para conformar estabilidad ustedes se autoexcluyeron nadie les ha echado ustedes se autoexcluyeron del diálogo para conformar la estabilidad hemos oído un discurso a mi modo de ver anclado en el pasado no ha querido entender mi discurso como le he dicho antes

en campaña y yo creo sinceramente que no está entendiendo los nuevos tiempos se

sí en el orden político económico social pero también en el orden de lo que es autogobierno de más y mejor autogobierno en cuanto al terrorismo

creo que no se ha dado cuenta de que en el exterior de esta cámara no hay dos leones no hay dos leones sino una escultura en homenaje a las víctimas del terrorismo y de la violencia y que aquí la mayoría de los grupos parlamentarios estamos trabajando también por lo que es el respeto

y lo hago porque usted ha identificado mi intervención en relación a eta como que no he considerado a eta como una organización terrorista le invito a que relea mi intervención

en cuanto a las políticas sociales hombre ustedes como partido popular que han provocado todos los recortes en el estado español señor alonso nos vienen a dar lecciones a los demás

que ha conseguido consolidar los servicios esenciales de las políticas públicas sociales usted pretende una euskadi

mire a mí no me gustan las comparativas con españa entre otras cosas porque siempre he defendido que lo que euskadi hace es una aportación al conjunto del estado y por lo tanto los datos que se puedan resumir de la situación del estado son aquellos en los que también está incurso o está afectada la propia comunidad autónoma de euskadi

a otros países pero en cualquier caso hombre

en renta por habitante en empleo en industria en ayudas sociales

creo que si vamos a una comparativa con el conjunto del estado nuestra comunidad autónoma la comunidad autónoma del país vasco sale yo creo que

le recuerdo además que cambiaron la constitución ustedes cambiaron la constitución para recortar el gasto público y para limitar el déficit fueron ustedes junto con el partido socialista obrero español quienes lo hicieron

de esa decisión promovida por el partido socialista obrero español en su momento y por el partido popular en cualquier caso señor alonso recojo recojo su oferta de colaboración

el envejecimiento de nuestra sociedad y ante ello también la necesidad de considerar como yo lo he hecho en la intervención de esta mañana esta cuestión como una cuestión de país

y ante lo que es la crítica también a lo que es el modelo de sociedad y a las prácticas de política sociales que el partido nacionalista vasco haya podido defender

en el acuerdo con el partido socialista yo le invito a que busque usted una comunidad en nuestro entorno en nuestro entorno sí sí que busquen ustedes una comunidad en nuestro entorno con mayores prestaciones sociales y con mejores servicios públicos le invito a que busque usted evidentemente hay que mejorar por supuesto que sí y eso es lo que he dicho esta mañana eso es lo que he dicho esta mañana señoras y señores de elkarrekin podemos que están gesticulando sí

como ejemplo y objetivo de lo que debería hacerse en españa y de momento señoras y señores de elkarrekin podemos que están federados o asociados a podemos españa no sé cómo será la decisión definitiva de si se

no han hecho en aquellos lugares en los que gobiernan ninguna aplicación de las políticas públicas sociales que pueda ser comparable a la que nosotros hacemos en la comunidad autónoma

ni una palabra en positivo ni una palabra en positivo no del gobierno sino de euskadi de la situación en euskadi ni una palabra en positivo ni una palabra en positivo del país en el que vive porque me ha dado la impresión de que intervenía usted o tenían una intervención de un país que no es en el que vivimos todas y todos

pero en los grises también hay también otras gamas

y creo sinceramente que estamos por ejemplo

pymes formación apoyo a la exportación de la que usted no ha hablado nada creo que tenemos también posibilidades de hablar comunidad autónoma de referencia en cualquier caso tal y como le he dicho al señor alonso también recojo su mano tendida especialmente en el autogobierno ya que

la bancada del partido nacionalista vasco del grupo parlamentario nacionalistas vascos ha hecho un ofrecimiento a eh bildu ha hecho un ofrecimiento al partido socialista de euskadi

la mano tendida en cuanto a lo que pueda ser un trabajo compartido en autogobierno

contamos con un proyecto nuevo no continuista ambicioso y concreto a los hechos me remito

nuevos retos y objetivos no hay conformismo en nuestra actitud todo lo contrario hemos adquirido nuevos y ambiciosos compromisos en todos los terrenos y les cito en el terreno económico nuevo programa marco de empleo y reactivación económica con mayor dotación presupuestaria de los seis mil setecientos millónes de la legislatura pasada

modernización de lanbide plan integral para la industria vasca apoyo a las pequeñas y medianas empresas autónomas

lo he desarrollado en la intervención de esta mañana en el terreno económico en el terreno social compromiso por fortalecer el sistema de servicios sociales garantía de las ayudas de emergencia social pacto por la familia y la infancia

compromiso para atajar la pobreza energética en el ámbito del desarrollo humano y la cultura propuestas para dinamizar y promocionar la cultura kultura auzolanean apoyo

extensión social del euskera a través de la agenda estratégica inserción laboral

incremento del parque de vivienda en alquiler para la juventud hemos planteado un proyecto

setenta y dos compromisos en desarrollo humano integración social igualdad y servicios de calidad cuarenta y tres compromisos en empleo en reactivación en sostenibilidad hemos planteado compromisos para la paz convivencia y derechos humanos necesitamos cerrar

y hacerlo de una forma ordenada hemos planteado también compromiso con más y mejor autogobierno

euskadi necesita más y mejor autogobierno ustedes que buena parte del partido popular es heredera

ustedes se sumaron al estatuto diez años más tarde

y en este sentido no es echar las culpas a nadie no es echar las culpas a madrid es respetar respetar lo pactado y defensa del autogobierno sí frente a la recentralización del estado y del gobierno español del partido popular señor alonso completar el estatuto lo he reivindicado

pero no lo hace en españa ni ustedes tan siquiera lo hacen en españa hemos hablado de la ponencia de autogobierno para consensuar un nuevo pacto estatutario de futuro un acuerdo institucional plural e integrador lo he dicho esta mañana también plural e integrador ratificado por la sociedad vasca y en autogobierno quiero destacar un compromiso relevante avanzar en la gestión de las políticas pasivas de empleo

y planteamos al estado la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social y la negociación en el seno de la comisión mixta de transferencias como corresponde de los correspondientes convenios que regulen la cita transferencia hemos debatido sobre esta cuestión también en la legislatura pasada

y lo haremos de conformidad con el artículo dieciocho punto dos y la disposición transitoria quinta del estatuto

yo creo que hay un territorio de consenso por explorar pero hemos planteado compromisos claros hemos planteado compromisos claros como el de la atención a las víctimas y la memoria

hemos planteado la necesidad de una reflexión crítica sobre el pasado el final ordenado de la violencia y la disolución definitiva de eta

y el compromiso con los derechos humanos contamos con una estrategia dos mil veinte para avanzar con mayor confianza no es lo mismo

no es lo mismo continuismo que dar continuidad a una estrategia eficaz y en eso sí me comprometo a seguir dando continuidad

con bases sólidas para responder a la prioridad que es crear más y mejor empleo con bases sólidas para garantizar las políticas sociales y los servicios públicos con bases sólidas para mejorar la calidad de salud educación y protección social

nuestro compromiso es construir un país justo y competitivo y nuestro objetivo es extender la cultura del acuerdo

este acuerdo de gobierno suscrito entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi es un acuerdo de país todo acuerdo de gobierno también es un acuerdo de país

extender el acuerdo somos conscientes de la necesidad de ampliar el diálogo de ampliar el consenso y de ampliar el pacto y esta es nuestra voluntad y reitero que compartimos una visión plural de la sociedad vasca que compartimos

garantizar la estabilidad institucional para el conjunto del país que compartimos la necesidad de la apertura al diálogo y el acuerdo con el resto de formaciones políticas

plena y así va a seguir siendo pero miren hemos remitido el mismo documento de diez ejes a los cuatro partidos políticos lo ha explicitado la señora

la respuesta o no que le ha ofrecido podemos y la respuesta o no que le ha ofrecido el partido nacionalista vasco a eh bildu pues bien yo también tengo que decir que el partido popular no quisieron responder el partido popular y podemos se autoexcluyeron del diálogo no entiendo la negativa del partido popular a hablar no entiendo cuando rajoy insiste en una nueva era de diálogo y acuerdo no entiendo que se vuelvan a cerrar

como lo es la política económica la política social la política fiscal

porque de eso también hemos adoptado acuerdos en la legislatura pasada

y en relación a eh bildu eh bildu afirmó que la sociedad los había situado en la oposición y lo ha dicho públicamente

entonces la disposición al acuerdo la crítica por no haber alcanzado un acuerdo con el partido nacionalista vasco cuando ustedes eh bildu han sido quienes han dicho públicamente que la sociedad les había situado en la oposición la eligieron a usted señora maialen iriarte como candidata al inicio de la negociación

que esperáramos que a dónde íbamos tan rápido cuando ni siquiera habíamos iniciado

de euskadi eh bildu ha hablado de su disposición a los acuerdos de país y me lo plantea también y yo he sido muy claro

y desde hace ochenta años este país se construye fundamentalmente desde el gobierno yo entiendo

la democracia representativa la democracia representada en este parlamento la democracia que representamos

yo no estoy dispuesto a aceptar el juego en emulación a otras estrategias que se hayan seguido en otros entornos no estoy dispuesto a emular el juego

yo lidero lo que pueda ser un proceso si no estoy en el gobierno y estoy en la oposición tenga que ser la sociedad la que lidere cualquier proceso no

ya le dije tengo mis dudas de dónde va a quedar el señor mas

acuerdos que no garantizan estabilidad lo ha dicho la señora larrion en relación al autogobierno

el modelo cup no es bueno para euskadi es inestabilidad y es tensión permanente

ni en la estrategia ni en los objetivos ni en la actitud por cierto

ha sido el único partido político la única formación política que ha presentado una propuesta concreta en enero y en octubre del año dos mil quince en relación a lo que debería ser el modelo de autogobierno a debatir entre todas las formaciones políticas intentar consensuarla nuestra mano está tendida planteamos un gobierno abierto al acuerdo y a la colaboración hemos encontrado

que nosotros hemos presentado a todos los partidos políticos coincidencias programáticas y hemos encontrado también coincidencias en propuestas concretas

es fundamental y quiero subrayar nuestras coincidencias garantía de las políticas sociales sin recortes mejora paulatina de la calidad en salud y educación

en innovación en apoyo a las pequeñas y medianas empresas y autónomos en internacionalización de la economía apoyo al comercio apuesta por la industria los nuevos sectores señora larrion cómo que el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco anterior no han tenido una política industrial

me parece que usted tiene que repasar mucho de los diarios de sesiones en esta cámara en la legislatura pasada y en todo caso de los planes estratégicos que ha aprobado el gobierno vasco y del programa marco de reactivación económica y de empleo y de generación de empleo suscrito entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco no le suena a ustedes lo que hemos dicho tantas veces de las cuatro

dónde están los datos de las nuevas empresas creadas dónde están los datos de lo que es la evolución del peso de la industria en el producto interior bruto que usted ha criticado señora larrión

también compromiso euskadi avanza por el buen camino yo conozco y reconozco los problemas no los oculto

y con sostenibilidad futura me he referido al esfuerzo de la sociedad vasca y llevamos cinco trimestres creciendo por encima del tres por ciento y creando empleo en dos mil diecisiete podemos recuperar el producto interior bruto que teníamos antes de la crisis ahora bien

mantenemos el objetivo de recuperar todos los empleos perdidos durante la crisis y nuestro gobierno mantiene su compromiso realismo verdad y trabajo agradezco el esfuerzo realizado por el partido socialista de euskadi para compartir un programa y le agradezco su confianza señora mendia tenemos la responsabilidad de demostrar que el acuerdo entre diferentes

además de posible es positivo para la sociedad y para el futuro de nuestro país

gracias señora presidenta señor urkullu yo la verdad es que le veo con la piel cada vez más fina y más fina que cuando yo le había tratado antes y la había conocido

mañana va a ganar la votación y va a ser elegido lehendakari de nuevo y por tanto es un honor casi motivo de estar contento y de tener ya una capacidad cierta de encaje alguna crítica le tiene que caer como es natural pues la legislatura será así y

y naturalmente criticamos para construir pero hay que tener la piel menos fina porque si va a usted

por decirlo coloquialmente un campeón pero vamos hay que tener también la misma capacidad de encaje que el primer día

pero euskadi es muchísimo más que usted y euskadi es mucho más de lo que usted piensa también

gente que tiene otra vivencia nosotros creemos que esta cámara debe representar eso como todas las cámaras democráticas no hay en ese sentido que tener miedo al debate

para no autoexcluirse hay que hacerse nacionalistas todos pues nosotros no somos nacionalistas y somos vascos y representamos esa posición y es una posición

naturalmente para avanzar por tanto yo en ese sentido creo que usted tiene que acoger con deportividad con buen tono y con ganas de aprender el debate que se plantea en esta cámara tener la piel más fina y yo creo que tengo hacer lo mismo y lo haré lo intentaré de verdad oiga es que usted no quiere dialogar yo hasta el amanecer lo que necesite lo que haga falta

yo que es mi primer día en el parlamento es verdad que he visto mucha rotonda lo he visto yo no entendía muy bien yo conocía el chiste de la rotonda de la gente que llega decían a vitoria y quedaba atrapado en una rotonda yo como soy de vitoria

y yo le recomiendo a usted también lo mismo y me ha parecido entenderle que usted no se quiere meter en la rotonda si no encuentra por donde va a salir

su paso y para que pueda funcionar pero no entendía muy bien cuando han empezado a hablar esa metáfora ahora me doy cuenta hay algunos que efectivamente

a las mismas cosas permanentemente y no es lo que yo he venido a hacer aquí ni lo que quiere hacer

de una manera correcta ordenada y bajo naturalmente el cumplimiento de la ley y de ese principio de pragmatismo que tantas veces se invoca y además ya sabe a dónde lleva hacer una cosa

y que yo veo cómo es el país vasco y que vive una situación mucho mejor que otras comunidades de españa muchísimo mejor incomparablemente mejor tiene capacidad de prestar servicios que otros no tienen

ayudas y apoyo a la gente que lo pasa mal que otras zonas de españa otras regiones de europa no tienen

con capacidad de competir que es una posición realmente buena para poder liderar para sacarle chispas

hombre me da un poco de salud me da un poco de apuro si tengo que criticar la sanidad vasca si es que me parece muy buena

y naturalmente su trabajo es ver qué es lo que falla qué es lo que falta dónde podemos mejorar porque también hay que pensar en qué es lo que cada uno aporta

hace cuatro años también estaba mucho mejor que los demás la pregunta es qué hemos hecho para que en estos cuatro años avance todavía más

esta es la pregunta y la pregunta es concretamente usted y su gobierno qué aportan qué pueden aportar para que esto avance y a mí me parece

de compartir mis ideas que ha habido dificultades para dar un salto adelante las dificultades que es verdad proceden de la propia situación de crisis económica

y financiero que hemos atravesado en los últimos cuatro años y que conocemos muy bien y es verdad que esa es una situación dada y dificultades que usted ha reconocido hoy aquí

y que solamente en el último tramo de la legislatura pudo maquillar un poco el marcador aprobando ocho leyes

como resultado de la gestión de la iniciativa legislativa de su gobierno en esta cámara

y por tanto no pueda aprobar cosas con otros grupos que a ustedes les deje en una situación perentoria o de necesidad y qué más

a dar estabilidad y que no haya motivo para que esos programas no puedan salir adelante ahora

para poder hacer ese trabajo con ustedes y colaborar

si usted es ambicioso tiene mayoría y si usted tiene ganas de hacer podemos hacer

a dar vueltas entonces va a ser imposible porque yo soy de vitoria y los de vitoria no morimos ni perecemos en las rotondas encontramos la salida

y por tanto espero que sí espero que los que vengan a vitoria los que vengan a vitoria este era el viejo sketch

por tanto esta es mi voluntad y el trabajo que se lo digo con muy buen tono porque además si es un día alegre para usted mañana y le he felicitado y le he dicho pero hombre

es que en la negociación por goleada ha ganado por goleada han sacado ustedes todos los planteamientos todo viene ahí yo ya lo había leído en documentos del pnv en el lenguaje la forma

y los ha seducido absolutamente al partido socialista de euskadi y no les importa ya que podamos estar aquí hablando

que se siente vasca española que quiere a la constitución y que quiere que todo lo hagamos

no vamos a aceptar que se nos autoexcluya no porque esa es la autopista y carretera

por la que circulamos hacia el futuro no pero escúcheme

que es con un tono más amable después de todo este día de negociación y de debate creo que podemos hacer cosas juntos

si se va por ese camino y me preocupa mucho la parte de su acuerdo que se refiere al autogobierno por el camino que también

espero que no sea esa sinceramente por eso me parece que estamos en un punto

muy brevemente porque ella habla del miedo que sienten las mujeres y es verdad muchas tienen miedo

y claro cómo no sentir sensibilidad hacia ese miedo y solidaridad

y entender que hay una causa profunda en una concepción estructural desigual de nuestra sociedad que lleva a esas situaciones de dominación de las que sale el miedo y en eso estamos de acuerdo verdad pero también le quiero decir yo he conocido a mucha gente con miedo yo he tenido mucho miedo

el miedo que claro que quería llevar a la marginalidad que es donde sus compañeros que no eran sensibles al miedo quisieron llevarnos siempre a la marginalidad

de la decencia de la lucha contra el terrorismo de llamar a las cosas por su nombre y de defender a las víctimas no será marginal nunca ni lo ha sido cuando lo intentaban a punta de pistola llevarnos a la

ni lo va a ser ahora y esa es mi convicción y seguiremos trabajando para que haya una memoria de justicia en esta tierra sobre las víctimas del terrorismo y lo que aquí ocurrió y seguiremos trabajando para que los que se tengan que mover sean aquellos que han venido apoyando al terrorismo durante tantos años y causando tanto dolor

yo creo que algunos de los grupos de esta cámara se han confundido de debate porque hoy hemos venido a elegir un candidato

en base a los proyectos que han expuesto y yo ya he adelantado la posición de los socialistas vascos que es que vamos a apoyar al candidato al señor

nuestro apoyo porque en el proyecto que ha presentado hoy en esta cámara

porque tiene una propuesta blindando los servicios públicos extendiendo los derechos sociales apostando por la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y también porque en acuerdo que hemos sellado se las bases éticas para construir la convivencia de este país en los próximos años y también porque la actualización del autogobierno se quiere hacer por la senda de la legalidad pero también por la senda la búsqueda de consensos amplios

al acuerdo firmado pero de manera sorprendente luego a la hora de escuchar el desgrane de las propuestas o de las ideas de cada uno de los grupos y luego también leyendo las propuestas que todos y cada uno de ustedes han ido registrando en estos días que lleva esta cámara abierta

que están en el acuerdo temas de ayudas sociales de la reforma de lanbide de oportunidades para los desempleados de larga duración de la reforma fiscal de la lucha contra el fraude del euskera de la garantía de los derechos subjetivos de la convivencia de la autogobierno en fin que yo lo que he visto en esta cámara hoy hasta el momento es mucha pose mucho aparentar pero luego probablemente les ha traicionado el subconsciente porque muchos de ustedes han pasado dos meses tertuleando

especulando sobre el acuerdo igual el acuerdo que hemos firmado

pero yo me voy a quedar con lo positivo porque creo que va a ser una legislatura

así que creo que arrancamos con mucho más que los treinta y siete parlamentarios que tenemos pero más allá de tremendismos

con un buen pie con un terreno allanado y creo que hemos acertado quienes hemos sido capaces esta semana de asentar el suelo común de establecer las prioridades que tiene este país y plantear soluciones porque parece que

en su grupo y en su discurso por un lado he visto que

y luego por otro lado en su discurso le he escuchado renegar de la capacidad de endeudamiento como

me he quedado bastante descuadrada porque eso lo considero que es mucho más propio de políticas de derecha y sí parece como

y lo quiere tener como ejemplo yo quisiera recordarle como empieza el estatuto de mil novecientos treinta y seis

con arreglo a la constitución de la republica y el presente estatuto

para el estatuto y para la renovación del autogobierno y señor alonso espero que en los próximos meses esté un poquito más ubicado en la política vasca porque le he notado un poco desubicado sobre todo

viniendo de donde viene que viene de un gobierno pues que nos ha recortado el autogobierno

viene de recortar la sanidad y la educación públicas viene de amenazar también con la reapertura de garoña y viene sobre todo de un ministerio que lleva el nombre de igualdad pero

décadas en derechos y en términos generales así que usted se presenta como alternativa yo la verdad es que permítame que dude que pueda ser alternativa

sí me gustaría hacer algunas aclaraciones porque usted ha dicho señor alonso que ha leído con mucho detenimiento los documentos

que están registrado en esta cámara nuestro programa electoral pero también le invitaría a que hiciera una relectura de la constitución de mil novecientos setenta y ocho donde define nacionalidades y regiones y también visite la web del consejo de europa y lea los textos sobre el término nación y su definición como nación cultural porque hay que recordar que en el mundo hay

pero no llegamos a doscientos estados por lo tanto es una realidad pero en cualquier caso los debates nominalistas no nos van a enredar porque para nosotros el autogobierno fundamentalmente es una herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos y para defenderle por ejemplo a políticas de derechas y yo creo que hay si en este país como hay diferentes sensibilidades diferentes identidades si podemos encontrar un suelo común

autogobierno para que la vida de los vascos y de las vascas sea mejor podamos tener nuevas herramientas para mejorar nuestro autogobierno para hacer políticas nuevas para blindar los derechos que hemos conquistado en estos últimos años pues yo creo que si ese término vale para encontrar ese suelo común creo que cabe precisamente

sino porque lo dice también el constitucional y porque un compañero insigne de su partido

identificó allí en la época constituyente nacionalidad y nación en el debate constitucional y con respecto en el derecho a decidir nosotros los socialistas estamos donde hemos estado siempre

que sean legales y donde los ciudadanos sepan sobre todo las consecuencias de su decisión porque tenemos además ejemplos dramáticos recientes acabo de leer ahora mismo el coste aproximado que calculan en el gobierno del reino unido que tiene el brexit

esa es nuestra obligación buscar acuerdos buscar suelo común

no tenemos que trasladar los problemas a la ciudadanía sino que nosotros tenemos que ser capaces de hacer propuestas que solucionen los problemas de la gente

en este parlamento se ha hablado ya en la legislatura pasada señor alonso en la ponencia se ha hablado de todo del autogobierno hacia dentro hacia fuera del derecho a decidir de la independencia en fin

como no puede ser de otra manera en democracia y sobre todo ahora que estamos en ausencia de violencia por fin

de todo y eso pues ya se sabe los socialistas no respaldaremos nunca ninguna propuesta que divida a esta sociedad y usted hablaba de la debilidad del partido socialista frente al nacionalismo pues eso debió de pasar también cuando

decía que había conseguido más en quince días con el señor aznar que once con el señor felipe gonzález

del movimiento vasco de liberación nacional yo creo que los socialistas vascos no hemos bajado nunca la cabeza ni cuando se intentó terminar y dividir la sociedad vasca

un favor a españa teniendo en cuenta cómo han dejado ustedes el estado de cataluña de ruptura y eso ha sido fruto de su política o de su no política diría yo así que espero que recapaciten y señora zabala

que representamos los otros sesenta y cuatro parlamentarios de la cámara

de esta cámara y eso a mí me parece que es muy peligroso yo espero que tengan ustedes ideas aportaciones nuevas a este parlamento se ha ofrecido a presentar propuestas socialistas pues me alegro seguramente nos encontraremos muchas de ellas están recogidas en el acuerdo de gobierno así que seguramente que será muy fructífero

legislatura que termina déjeme un poquito de tiempo vale a partir de hoy vamos a decidir sobre el futuro de euskadi

de los próximos cuatro años vamos a hablar de la próxima generación y todos los grupos están convocados a ello este veintitrés de noviembre

votaremos lo que consideremos pero en las próximas semanas vamos a decidir sobre muchas cosas vamos a decidir sobre la calidad del empleo por ejemplo sobre el papel que queremos que tengan las mujeres sobre la lucha contra el fraude contra el fiscal y contra el que se pueda

al margen de la solidaridad que necesita o sobre cómo devolvemos a euskadi a la cabeza de europa en innovación o sobre cómo nuestros trabajadores y trabajadoras recuperan derechos y se alejan de la precariedad o sobre cómo recuperamos a quienes llevan más de dos años en el desempleo

para hacer que todo eso sea posible vamos a decidir si todo eso lo queremos construir sobre bases éticas irrenunciables que renieguen de cualquier horror del pasado

y nadie sobra nadie en esta cámara sobra todos sumamos en ese camino y lo importante es que cada parlamentario y parlamentaria cada grupo sepa cuánto tiene que aportar

creo que hoy cambiamos de ciclo es la convicción socialista no porque nosotros vayamos a compartir responsabilidades de gobierno sino porque es la primera vez en la historia de los vascos

como paso previo a encontrar un proyecto juntos sin que haya por detrás una amenaza un riesgo de bomba ni de tiros en este país tenemos una oportunidad no es para dar continuidad a nada es para intentar dar precisamente un salto al futuro para hacer política y hacerla en este parlamento hoy muchos nos miran desde fuera de euskadi hasta hace bien poco nos miraban por el terror que nos sacudía y hoy lo hacen porque hemos sabido encontrar una vía vasca

arratsalde on lamento que la pluralidad que hoy se pone en valor respecto

no se tuviera en cuenta hace unos meses cuando se celebró los actos oficiales de aniversario y se ignorase precisamente parte de aquella pluralidad a

en cualquier caso y ante las candidaturas que se presentan hoy decir que desde parte del grupo parlamentario la parte

consideramos que queríamos construir la alternativa al partido nacionalista vasco emplazábamos aquel día a eh bildu y al partido socialista

contamos con mayoría parlamentaria suficiente para plantear una alternativa por la izquierda lamentablemente ninguna de las dos fuerzas a las que nos dirigimos nos recogió el guante en aquel momento y al contrario prefirieron intentar armar acuerdos con el partido nacionalista vasco

un acuerdo de gobierno mediante el cual en nuestra opinión el partido socialista ha decidido ser muleta del pnv en vez de buscar esos acuerdos por la izquierda

al partido nacionalista vasco la cosa en nuestra opinión es mirar a la derecha y no a su izquierda no vamos a apoyar como ya se ha dicho la candidatura de iñigo urkullu porque no compartimos su modelo de país no compartimos su modelo país basado en una fiscalidad

sobre la más que castigada clase trabajadora no compartimos su modelo de externalizaciones de los servicios públicos que supone mayor gasto

no compartimos algo tan importante como el modelo educativo que sitúa a euskadi como la comunidad autónoma que más dinero destina proporcionalmente a subvencionar la enseñanza privada

apellido vasco a las cosas sino que creemos que tiene que ser en este caso público gratuita y de calidad

con competencias por ejemplo en materia de inspección de trabajo la precariedad laboral campa a sus anchas donde miles de trabajadoras y trabajadores sufren condiciones laborales penosas y jornadas

yo vengo de descargar camiones cincuenta y pico horas a la semana por novecientos euros aquí en mi tierra en euskadi quizás por eso

hincapié en las cosas negativas porque venimos desde nuestra propia realidad he de decir que nos hubiera gustado que eh bildu hubiera tenido claro desde el principio

no es posible alcanzar acuerdos de gobernabilidad con el pnv si se quiere que los contenidos de esos acuerdos sean en favor de la mayoría social trabajadora hubiéramos preferido

les décimos que nos alegramos de que se sitúen ahora ustedes claramente en frente del señor en la construcción de esa alternativa desde la izquierda nos podemos encontramos sin duda y lo haremos aquí

nos encontraremos en políticas de izquierdas nos encontraremos

desde luego en el derecho a decidir ustedes supongo que para construir la independencia y nosotros desde luego para intentar construir la tercera república

no obstante creemos que no es de recibo que después de haber estado casi dos meses intentando buscar un entendimiento con el partido nacionalista vasco nos dijesen a falta de unos días para la investidura que como no se han entendido con ellos ahora les tenemos que dar nuestro voto y el documento que nos entregaron no nos lo plantearon para que le apoyásemos en la investidura nos lo plantearon para trabajar durante estos cuatros años y así lo entendimos al menos

de nadie finalmente dirigirme al partido socialista

apoyar al gobierno nacionalista en vez de situarse también en esa alternativa que planteamos

y los de sí a la monarquía en cualquier caso hubiéramos preferido encontrarnos con ustedes

al gobierno del partido nacionalista vasco los parlamentarios de ezker anitza izquierda unida y el conjunto de la coalición de la que formamos parte vamos a trabajar con contenido programático al servicio de la mayoría social trabajadora

por eso nuestra posición hoy es la de confrontar y no apoyar la candidatura

y la de empezar a construir la alternativa progresista para euskadi que hoy todavía no se ha podido construir en esta cámara eskerrik asko

esos dos objetivos mostrarnos una serie de cuestiones vagas

y bloquear una mayoría progresista que insistimos que existe

sí que hemos de reconocer que por lo menos una de las partes nos ha traído un proyecto en que concretan una serie de medidas

porque lo estamos trabajando en profundidad para poder desarrollar cuestiones muy concretas

por tanto como veo que nos va a ser difícil

y espero que el señor egibar cuya capacidad de respuesta es ya

sobre el proyecto que habéis traído hoy aquí la primera pregunta que es verdad

quién le ha puesto el nombre al acuerdo porque tanto

solo que sin el bueno y sin el bonito pero ya una vez preguntado esto vamos a entrar a lo que realmente

empleo el empleo es la mayor preocupación que tiene la ciudadanía vasca

legislatura el empleo que no el desempleo porque al fin y al cabo lo que le preocupa a la gente no es tanto no encontrar trabajo sino que el trabajo que encuentran

y no les garantiza unos derechos de vida básicos plantean ustedes que vamos a bajar o va a bajar este gobierno el paro con las tasas más bajas del diez por ciento

mediante empleo de calidad jornadas completas puestos fijos o simplemente van a medir a peso cuántos empleos que perpetuán el precariado se han creado y con eso se dan por satisfechos a peso como la mayoría de los números que aparecen en su acuerdo apuestan ustedes también por un plan específico de empleo juvenil pero vamos a apostar también por el retorno de la juventud emigrada por razones económicas

que siquiera tal fenómeno existe o incluso invitándoles a marcharse también tenemos una pregunta para el partido socialista no crean que se van a librar solicitan el traspaso del régimen económico de la seguridad social bien pero

apuestan por la captación de proyectos de inversión extranjero con o sin condiciones de permanencia

a precios competitivos también hablan de favorecer el desarrollo de proyectos industriales estratégicos están hablando de subvenciones encubiertas a gran capital no os recuerda esto un poco lo que ha ocurrido en arcelor y así

en este acuerdo y fíjese que solo hemos hablado de una parte muy breve que hemos hablado de empleo y aunque tengo unas cuantas partes preparadas pues voy a coger un minutito y medio más pero no me va a dar para plantear

lo que quería hemos echado algo bastante en falta la palabra pública hablan ustedes de una ley vasca de educación una ley vasca de educación o lo que necesitamos es una ley vasca de educación pública

al mismo nivel de educación hablan de impulsar medidas específicas para corregir la diferencia existente entre la red de centros públicos y la red de centros concertados

es una diferencia o una consecuencia de un mal reparto de fondos a la concertada frente a la pública más preguntas

y lo mismo que hay que diferenciar que los avances de país no se deben solo al gobierno vasco también hay que diferenciar el papel de la realidad

y que nos de muchos nombres de programas no significa que haya un proyecto detrás

falta proyecto y falta política porque usted lo ha dicho dónde están los resultados de la dónde están nunca vemos los resultados y hay resultados

absolutamente todos somos capaces de hacer y que este gobierno habrá hecho cosas pero no ha hecho las suficientes horretan esaten dugu autokritika beharrezkoa dela baina aurrera egiteko

es catedrático de la izquierda abertzale en historia de la izquierda abertzale

pero les tengo que decir algo tienen que adaptarse a la realidad formen a alguien en historia moderna en frentes amplios y que también se forme en euskal herria bildu

yo desde luego he comentado que había que dejar las trincheras y valoraba positivamente el planteamiento que hacían a la mañana pero esta tarde han amagado con volver

y aquí también también aquí la sociedad nos ha tomado la delantera afortunadamente y perciben y así lo dice en el sociómetro que los partidos somos un obstáculo en este avance

no importa si conseguimos avanzar pero vuelvan al discurso de la mañana compañeros y compañeras de podemos claro que nos encontraremos porque aquí es posible porque nosotras también queremos construir la república vasca

y creo que hay bastantes más posibilidades de que hagamos la república vasca que la tercera república que ustedes pretenden pero no tendríamos ningún problema en acompañarles hablan de contenido programático y por eso yo también tengo una pregunta porque escribía nagua alba

quienes celebramos aquel escaño dieciocho y las posibilidades que habría no desaprovechemos esta oportunidad señor martínez yo tengo una pregunta qué parte qué parte qué parte no les ha gustado qué parte hace que vayan a tener la misma actitud

neoliberal que nos está presentado el señor urkullu y al proyecto avanzado y de izquierdas que nos ha presentado la señora iriarte qué parte no les ha gustado

planteamiento de pensiones qué parte cómo van a poder ustedes justificar que las posibilidades que se abrían las han desaprovechado

ustedes y habrá que hablar un poquito de saltos ustedes presentaron una propuesta en la ponencia de autogobierno nos ha dicho y fueron los únicos vaya yo lo que veo es que fueron los únicos que prometieron una consulta en el dos mil quince

ha dicho usted que fueron los únicos que presentaron una propuesta en la ponencia de autogobierno

también en esto se confunde señor urkullu y creo que se confunde porque no creo que haya querido mentir

dónde está en este caso cuando decía que eran los únicos su principio de realidad dónde está y yo creo que su problema lo ha verbalizado cuando ha dicho cómo quedó más

y a lo mejor ese es uno de los problemas señor urkullu que esté más preocupado

efectivamente el lehendakari agirre partió de eso que nos ha leído y consiguió y eso es lo que yo he dicho partiendo de ese texto

eso es a lo que precisamente le he dado valor yo al lehendakari agirre ahí estaba precisamente

que él sí que se exilió por poner el principio democrático por encima del de la legalidad impuesta en ese momento por aquel golpe de estado fascista

que este país sea subalterno en el estado español eskerrik asko

eta aurre egin behar dela eta para no haya dudas si alguien tiene

maniobra de aproximación al pnv y os saca de la rotonda tranquilamente

esa es la realidad porque me decía podemos sobre el empleo he citado un ejemplo dela semana pasada también de la señora franco vuestra diputada que admite

y claro cuando estamos hablando de smi estamos diciendo muchas cosas si en el holanda esta mil quinientos en bélgica a mil quinientos en alemania hay mil cuatrocientos y nosotros tenemos

en seiscientos cincuenta y cinco y estamos hablando de un diferencial se solamente cuarenta euros con la renta básica

es evidente que estamos desincentivando el trabajar y lo que hay que subir es progresivamente el smi

porque claro no no me hace así pero en alemania en alemania

la renta está en trescientos treinta y nosotros no estamos diciendo

hay que subir progresivamente pero claro centralidad os indica y os obliga a negaros a la oposición hori da gertatzen dena adibide garbia

joan den astean gertatu da además el alegato fue el de que íbamos a practicar un dumping social

entonces se admite que todos nos igualemos a la baja pero no se quiere que nos igualemos a la alza por qué no se puede igualar a la alza porque la situación en andalucía en extremadura es diferente evidentemente pues que cada comunidad autónoma tenga competencia para decidir el smi es lo que decíamos nosotros

que de ahí surge una obligación y un imperativo democrático de tener que desarrollar el concepto del derecho a decidir

porque alguien le diga no no el partido nacionalista vasco lo va a liderar como lo ha hecho en otras ocasiones por cierto porque aquí se ha hablado de la cátedra de la historia de la izquierda abertzale pero mira en cierto momento

hubo una comisión de autogobierno también en la que estaba presente participaba oskar matute rafa larreina y por parte del partido nacionalista vasco elixabete piñol y yo mismo

y el partido socialista tenía a jesús eguiguren de representante y la izquierda abertzale a arnaldo otegi

muchas sesiones observamos que desde luego no había no había interés propositivo por parte del señor eguiguren

y en aquel momento por eso hay que tener un poco de conocimiento de historia en aquel momento prevalecía otro esquema

el pnv no importaba para nada no era necesario para nada

para qué el pnv si la llave del derecho a decidir y la de las cárceles está en manos del partido socialista de zapatero ese era el esquema

yo negocio directamente el pnv no me sirve para nada

tan es así si quieres te puedo pasar

del señor arnaldo otegui que no quería sacarla pero ya que empiezas a azuzar preferimos que el psoe gobierne a que lo haga el pnv

que suponen un buen guión para el diálogo que de la filosofía del plan ibarretxe

y aquí tuvimos una votación y zapatero que estaba en doñana el treinta de diciembre de dos mil cuatro

tranquilo que no sale al parecer algún socialista le transmitió

sobre el denominado plan o proyecto qué hizo tres votos a favor tres en contra y el séptimo estaba huido que era urrutikoetxea esa es la historia entonces yo lo que yo digo es que si vamos a actuar con lealtad